para decir que estamos a favor eskerrik asko damborenea jauna

idoia hasi zaitez mesedez mila esker egun on guztioi no voy a ser quizá tan breve como el señor damborenea pero prometo ser breve solo quería dejar

civil foral porque consideramos que hoy es un paso importante por muchas razones es importante porque aprobamos este dictamen por mayoría absoluta de la cámara

y aprobar una ley civil vasca en próximas fechas es importante también porque este dictamen confirma a este parlamento como órgano competente para reformar e impulsar la reforma

y hay que reconocer que si estamos en este punto tan cerca de una reforma de estas características es precisamente por el empeño de este parlamento que en las últimas tres legislaturas

y creando el clima necesario entre todos los grupos para que esta reforma pueda ser una realidad próximamente es verdad que las reformas legislativas que nos vienen desde la unión europea nos ayudan en este caso también a nuestro favor para que las figuras como la vecindad civil sean imprescindibles estas legislaturas de trabajo en este campo no han sido tiempo perdido a pesar de que pueda parecer mucho tiempo porque han servido para consolidar una visión común entre la mayoría de los grupos de la cámara

hacia el tránsito necesario de una modernidad que tenemos que abordar en el derecho civil foral modernidad en cuanto a la extensión de la vecindad civil foral

sin despreciar la posibilidad de que en el futuro fruto de ahondar en el estudio del mismo pueda hacerse una formulación actualizada nueva y común para todos los vascos también el convencimiento de que en esta tarea debemos contar con las aportaciones de los operadores jurídicos de los investigadores

y también que estos deben de ponerlos en común ante este parlamento evidentemente estas aportaciones tendrán que ser recibidas en un tiempo razonable y breve

presentaremos una proposición de ley civil tomando como base las mismas

una decisión que creo que es muy importante que es la creación de la comisión de derecho civil vasco como órgano consultivo al servicio del gobierno

que es muy importante que la cámara hoy apruebe con mayoría absoluta este dictamen nada más y muchas gracias eskerrik asko mendia

un grupo de personas de ideologías y sensibilidades diferentes recabando las aportaciones como se ha dicho de los diferentes operadores jurídicos investigadores y colegios profesionales del mundo jurídicos lo que sin duda generará un vivo debate

que permita configurar un texto que sea reflejo de una sociedad plural moderna y dinámica es necesario emprender una labor que permita hallar

y de esta forma establecer unas normas de carácter general para los tres territorios siempre bajo el respeto de las peculiaridades territoriales la nueva legislación no puede configurarse como una carga para la ciudadanía al contrario la libertad civil ha de ser el punto de encuentro

etxeak bere ardura como decía en euskara en ningún caso la futura ley agotará la tarea de investigar y promover el derecho civil vasco de ahí la importancia como se ha destacado de la creación de la comisión y la importante labor que deberá desarrollar

derecho civil vasco tampoco debemos perder de vista que el reglamento europeo de sucesiones será aplicable a partir de agosto del dos mil quince

para la entrada en vigor de este reglamento resulta más que conveniente contar con un marco normativo actualizado de nuestro derecho civil

respetando eso sí las particularidades territoriales bukatzeko gainontzeko taldeek esan duten moduan

con toda seguridad vivimos una crisis económica que ya nadie niega pero que es la más grave que ha azotado este país en la reciente historia de nuestra democracia una crisis cuyo principal efecto ha sido la pérdida de millónes de puestos de trabajo durante los últimos cinco años y el empleo constituye

además un factor de cohesión social imprescindible para cualquier persona que en caso contrario puede verse abocada a una situación de exclusión empleo

son derechos constitucionalmente protegidos que deben ir acompasados y armonizados

del resto como expresé durante la reciente interpelación las estadísticas pero detrás de cada una de ellas se encuentra una persona un rostro que ve como sus expectativas se ven frustradas tenemos por ello la obligación como representantes públicos de ofrecer una respuesta a todas esas personas a todas esas familias que actualmente

algunos han pretendido durante un tiempo hacernos creer que eso no iba a suceder en euskadi pero sin embargo no ha sido así lo vivimos en primera persona también aquí

que están sin empleo todos sabemos que muchas familias incluso están subsistiendo con la ayuda de sus padres o de sus familiares en euskadi son ciento setenta y ocho mil las personas que engrosan las listas de lanbide

poder hacer frente a sus gastos ordinarios y es evidente que los poderes públicos debemos

que ofrezcan una cobertura mínima que permita atender sus necesidades más perentorias pero no es menos evidente que nuestro objetivo como responsables

nuestro objetivo no debe de ser aspirar a ser una administración benefactora aunque es cierto

es para crear las condiciones de que los vascos puedan llevar una vida plenamente integrada y autónoma y para ello nada mejor que ofrecerles la posibilidad de poder acceder a un puesto de trabajo no es intención de este grupo poner en duda la voluntad del gobierno vasco en la búsqueda de este objetivo

no parece que vayamos por el camino adecuado y las cifras así parecen indicarlo nuestro objetivo con esta proposición consiste en contribuir

aportar ideas entre todos y podamos dotarnos de más y mejores herramientas que ayuden a mejorar las condiciones de empleabilidad de la sociedad vasca lo dije hace quince días

de que la buena gobernabilidad de euskadi era algo inherente consustancial

que asocia a este partido concreto con el buen designio también dije en ese momento se empieza a resquebrajar y comienza a ofrecer

en los últimos tiempos también se ha pretendido instalar la opinión generalizada de que la marca españa lastraba la pujante economía vasca y de que esta era la causa fundamental

y también hemos de decir y posteriormente lo argumentaré que esta justificación empieza a dar síntomas de desvanecimiento

en materia de empleo porque como decía algún dirigente nacionalista en euskadi gestionamos mejor que en españa pues bien

en el mes de marzo el gobierno vasco aprobó el programa de reactivación de empleo dos mil trece dos mil dieciséis este programa tenía como objetivos principales paliar la destrucción de empleo favorecer el mismo y la inserción laboral de la juventud potenciar la integración laboral de los más desfavorecidos e impulsar el autoempleo decían además que era un plan de acción y no de reflexión y que con su desarrollo se iban a crear

se hablaba también de que el programa era abierto y flexible y con voluntad de incorporar aportaciones y por último se expresaban que las medidas eran realistas medibles y cuantificables se nos dijo hace quince días aquí que esa cuantificación se podría ver cuando se presentase el plan

alguno de ellos tomando como referencia la tasa de desempleo interanual vemos que mientras que en el resto de españa

en euskadi ha aumentado en diez mil ciento ochenta y nueve en términos porcentuales a nivel nacional el desempleo

un seis coma seis lamentablemente somos la comunidad

según los datos correspondientes al mes de octubre el treinta coma siete por ciento de las personas menores de treinta y cuatro años

y en lo que se refiere a los autónomos en euskadi en los tres primeros trimestres del año

muchos de ellos por la falta de financiación bancaria que supuestamente el gobierno vasco iba a compensar mientras que en el conjunto de españa los autónomos han crecido el cero coma treinta y seis por ciento en euskadi han descendido en un uno coma treinta y seis por ciento como decía en estos tres primeros trimestres del año y lo decía presentamos esta iniciativa con vocación constructiva con ánimo de intentar aportar medidas que puedan ayudar a mejorar la situación de desempleo en euskadi así en la moción lo que pedíamos en primer lugar es que se trajese a esta cámara para su análisis los resultados obtenidos

nos parece imprescindible que los resultados que arroje sean conocidos por el resto

porque sería un ejercicio de transparencia y segundo porque puede ser una buena oportunidad para que el resto de los grupos que conformamos esta cámara podamos realizar aportaciones

dirigentes del departamento de empleo el programa tenía un carácter flexible abierto y con voluntad de incorporar aportaciones pues bien nada mejor que traerlo a este parlamento para cumplir con dichos objetivos y en segundo lugar solicitábamos que la ley de empleo que estaba prevista presentarse el primer semestre del dos mil quince

y nosotros lo que pedíamos es que se presentase el año próximo durante el primer semestre

a conseguir un acuerdo entre todos los grupos y en ara

lo que hemos solicitado en la enmienda que hemos firmado los cuatro grupos de esta cámara es que se adelante en la medida de lo posible la presentación de este instrumento legislativo porque consideramos que la situación en euskadi en materia de empleo exige respuestas ágiles y dinámicas entendemos que si para este gobierno el empleo es una prioridad como debe serlo

a tan largo plazo consideramos que es necesario que se adelante en la medida de lo posible la presentación de la misma algunos

y realizar una gestión adecuada de las mismas tenemos

que lo que piden es que pongamos el autogobierno al servicio

que gestionemos nuestras competencias con dinamismo y que demostremos eficacia

nuestros jóvenes nos están diciendo que no quieren irse fuera de euskadi que quieren quedarse y desarrollar aquí sus proyectos vitales

nos piden denodadamente que les brindemos una oportunidad nos dicen que le ofrezcamos un marco apropiado que les permita quedarse a vivir aquí en euskadi pero para ello necesitan un trabajo también nuestros autónomos nos piden ayuda y nos dicen que necesitan medios para no seguir cerrando sus persianas también las empresas necesitan medios para continuar con su actividad pero todos esos medios pasan por ofrecerle mayores y mejores herramientas y mayores y mejores dosis de oxígeno financiero

en la interpelación pues bien queremos que esa luz no deje de ser una entelequia sino que esa luz se encienda

creemos sinceramente que debemos actuar con premura con agilidad y con visión de conjunto

también en esta materia con el objeto de llegar entre todos a un gran pacto por el empleo que ayude a salir del atolladero en el que se encuentran a miles de vascos por ello

y por ello hemos firmado esta enmienda que desde aquí quiero dar las gracias a upyd al partido socialista y al partido nacionalista vasco

buenos días señor lehendakari nos encontramos ante una iniciativa en la que el pp vasco

sin duda y creo que es algo que estamos todos de acuerdo el problema fundamental que tenemos a día de hoy en nuestra sociedad el desempleo el crecimiento del desempleo el crecimiento del paro la crisis económica

miles de vascos el crecimiento de la desigualdad la situación de pobreza en la que se encuentran miles de vascos la situación de

la evolución definitiva de la economía en los últimos meses la evolución del paro en el último año lo cierto es que la enmienda de upyd técnica pretendía corregir un error el de la moción planteada por el grupo popular

plan de reactivación económica por plan de reactivación del empleo por lo tanto pretendía corregir

era técnica y finalmente hemos llegado a una transaccional yo creo que se trata básicamente de saber si los planes

actuaciones y medidas que anuncia el gobierno vasco y que pone en marcha también el gobierno vasco y que permanentemente el lehendakari

si efectivamente están obteniendo resultados óptimos o no cuáles son esos resultados que se están obteniendo como consecuencia de estos planes programas actuaciones que permanentemente se anuncian en distintas ruedas de prensa y también en este parlamento si deben revisarse y en qué sentido de modo que todos podamos realizar las aportaciones que consideremos para un objetivo compartido que es la creación

se trata por lo tanto de hacer un seguimiento de los resultados obtenidos en este caso por el programa de reactivación del empleo dos mil trece dos mil dieciséis que aprobó el gobierno vasco efectivamente tal como se ha dicho el programa prometía

para dos mil trece cifra que el gobierno vasco libremente señaló y que evidentemente no va a cumplirse

presentar planes o programas o verbalizar permanentemente promesas hay que analizar que se ponen en marcha reconocer los errores cometidos y tratar de corregirlos e incluso también asumir responsabilidades tenemos por lo tanto el programa de reactivación del empleo dos mil trece dos mil dieciséis pero tenemos también el acuerdo interinstitucional para la reactivación económica y el empleo

para conseguir una euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva que incluye a su vez un acuerdo para la reactivación económica y el empleo

hay que analizarlo y observar si efectivamente esto que permanentemente se nos anuncia por parte del gobierno o por parte de distintos partidos políticos si ciertamente obtienen los resultados que todos deseamos obviamente no todo depende de lo que haga el gobierno vasco

de lo que decidamos en este parlamento dependemos de europa nos influyen las políticas europeas nos influyen las políticas que se aplican desde el gobierno de españa nos afecta en este caso para mal la última reforma laboral

e impulsada por el gobierno de españa dependemos también de la fiscalidad que se aplica y que se aprueba en las juntas generales que desgraciadamente no se decide aquí sino como digo

de la propia capacidad de nuestras empresas como también se nos ha recordado en los últimos tiempos por parte del propio consejero de empleo la propia capacidad de nuestras empresas para modernizarse y adecuarse a los tiempos cambiantes y de otras muchísimas

de las políticas públicas en general que se aplican de los presupuestos generales del estado de los presupuestos vascos y también de las políticas

depende de un gran número de variables y en general de las políticas públicas que se aplican ya digo en europa en el conjunto de españa

de los territorios históricos pero al menos entendemos que habrá que analizar

que ustedes firman y aprueban para observar su eficacia y desde luego y esto es evidente no es responsabilidad exclusiva del

vasco se nos anunció como se ha dicho la creación de un fondo de seiscientos millónes de euros para financiar a pymes y autónomos que luego fue rebajado a trescientos y no sé si finalmente ha quedado en cien y toda una serie de promesas que

que se anuncian de manera pomposa en los diferentes medios de comunicación en ruedas de prensa pero que luego no obtienen los resultados que supuestamente

y si resulta que nos encontramos ante un gobierno vasco incapaz

al problema fundamental de los ciudadanos vascos mientras eso sí deroga

propone una ponencia de autogobierno o la celebración de una consulta para dos mil quince y si resulta que este gobierno realmente es incapaz de crear

relacionados con la creación de empleo pero y si resulta que es realmente incapaz de hacer frente a la situación de crisis económica en la que se encuentra no es cuestión de compararnos

o de compararnos con el resto de españa únicamente cuando nos interesa es cuestión de observar nuestras propias cifras y la evolución de las cifras cifras

que están recogidas también en la interpelación y son cifras también publicadas por distintos organismos oficiales

desempleados vascos que tenemos en la actualidad el gobierno vasco nos dice permanentemente estamos gobernando

tomando decisiones bien y los resultados dónde están decía el consejero que el empleo no se crea por decreto cierto entiendo que el gobierno vasco algo puede hacer es ciertamente curioso cuando se crea empleo es gracias al gobierno vasco y es porque tenemos un gobierno o un partido nacionalista vasco que sabe enfrentarse a la crisis económica cuando se crea empleo

a las políticas económicas impulsadas por parte del gobierno vasco cuando crece el paro cuando crece el paro y cuando no podemos hacer frente a la situación de desempleo creciente claro el empleo

las empresas yo creo que algo algo puede hacer el gobierno vasco es decir el gobierno vasco es responsable del crecimiento del desempleo no es el único responsable pero es un responsable absolutamente fundamental

decía el consejero en la interpelación que este plan referido al plan

un primer paso y tiene un impacto a corto y es paliativo no es un plan

no sé si esto fue lo que ustedes dijeron en rueda de prensa cuando presentaron el programa no sé si fue esto exactamente lo que dijeron quizás sí pero en todo caso si tiene un impacto a corto creo que ya estaríamos en disposición de observar cuáles están siendo los resultados obtenidos

curiosa claro cuando euskadi va bien es gracias al gobierno vasco

lo hacemos mejor y es gracias a las políticas que se aplican desde aquí pero cuando las cosas van mal el consejero de empleo dice exactamente que la economía vasca está estrechamente ligada la evolución del entorno económico estatal y europeo

evidentemente pero el gobierno a veces cuando las cosas van bien dice e insiste

es básicamente gracias a las políticas que se aplican desde aquí cuando las cosas van mal reparte culpas y no se trata de repartir culpas o quizás sí

nosotros también y también el gobierno cuando se crea empleo

incluso como la interpelación se hace referencia a las propuestas de resolución aprobadas en este parlamento en fin no me parece que sea demasiado serio en todo caso

nosotros también la nuestra y creo que la obligación de la oposición es presentar también propuestas y controlar las decisiones del gobierno yo creo que todo esto está básicamente recogido en la enmienda transaccional que nosotros hemos firmado con el resto de grupos y que por lo tanto saldrá se trata de que sirva para crear empleo y para enfrentarnos de la mejor forma posible todos juntos a ser posible a la crisis económica en la que estamos

es el problema fundamental que tiene euskadi a día de hoy gracias

lehendakari señorías buenos días la señora llanos nos trae hoy un tema bien interesante

tema urgente y que forma parte de un debate permanente sin embargo a pesar de la transcendencia del asunto la primera cosa que me vino a la cabeza y me van a perdonar la digresión fue una historia

mandó a los alumnos hacer una redacción sobre la navidad y que después de las vacaciones uno de ellos entregó un texto que decía así redacción de la navidad no salí de casa por qué me venía a cuento esto porque

es muy mala pero las hay peores y con eso seguramente

mi disertación pero no estamos hablando de políticas de empleo estamos hablando de incidir desde los poderes públicos sobre uno de los temas más

esto no es un asunto de broma ciertamente he leído con atención el debate que se suscitó y del cual trae causa

la señora llanos hizo un despliegue de datos sobre la realidad

y reflejar la realidad bajo su lectura eso no es demagógico eso es dar una impresión

y de aportes que podrán ser más o menos exactos pero que formalizan una argumentación se lo digo en recuerdo de alguna otra intervención es decir plantear las cosas con las cifras y datos es una forma de reforzar la argumentación y me parece bien

frase de contestación también de forma preventiva dijo hombre

nuestra intención nuestra intención es aportar en todo caso a las políticas de empleo coadyuvar para que estas sean eficaces y logren en definitiva el propósito para el cual se realizan claro hablar de políticas activas de empleo significa hablar de la estrategia europea de empleo tratado de lisboa etcétera

semejantes en unos casos y en otros sin embargo efectivamente luego el acierto atinar con ellas enfocarlas debidamente

vienen a demostrar más o menos el éxito o no de estas políticas básicamente las estrategias europeas de empleo que suscriben los estados miembros hablan de mantenimiento del empleo

mejora de la competencia capacidades profesionales reforzamiento de las prestaciones por desempleo y el apoyo a los hogares es decir

acciones inmediatas planes de choque que sería un poco también lo que interesaría analizar lo más inmediatamente posible cómo han ido esas medidas de choque y luego hay políticas activas de empleo que tienen más que ver con la formación que son más

en una onda larga por aquellos procesos de transformación tecnológica que vive la sociedad pero

siempre se puede dudar pero yo voy a poner un cuestionamiento previo sobre la voluntad y lo digo porque claro nosotros tenemos competencia en políticas activas de empleo pero esa competencia llegó a esta comunidad autónoma de una forma un tanto

si lo recuerdan ustedes y si no se lo recuerdo yo esta competencia llegó a través de unos movimientos perturbadores por los cuales no llegó en el primer año recordar que estábamos gobernando los socialistas baja la lehendakaritza de

y entonces había una transferencia casi pactada hubo que demorarla por una serie de acuerdos presupuestarios con el estado y luego vino eso sí con unas bonificaciones porque decía que

comprar mercancía averiada también sabemos que lo de las bonificaciones que forman parte de políticas de empleo

ya lo preguntaremos si es que no tenemos conocimiento posiblemente alguien quiera pensar y a lo mejor en la réplica alguien lo dice que en fin que volvemos a sacar cosas del pasado que es que estamos siempre con aquellos dimes y diretes no no es nuestra intención para nada pero es que hay que sacar las lecciones de la historia para saber realmente

qué importancia le da uno a estas cuestiones como políticas activas de empleo

no quiero perderlo de vista para analizar a continuación las demás cosas qué dijimos nosotros también porque aquí de lo que se trata no es de predicar sino de dar también trigo lo que hicimos los socialista fue inmediatamente de ser ejecutiva ese traspaso fue conformar

el gobierno nos ha dicho que efectivamente el hecho de que no exista una mesa de diálogo social no quiere decir que no haya diálogo bien

de aquellos acuerdos salieron también algunos programas algunas acciones en materia de empleo

pero también se pueden hacer de forma concertada mediante acuerdos tripartitos o bipartitos y aquella experiencia que llevaba a cabo

que el impacto de las políticas de empleo es siempre limitado sabido y se dice

la creación de empleo neto viene a partir de unos crecimientos etcétera

algunos sitúan que a partir de uno coma cinco del crecimiento del pib se crean empleo en fin

será verdad o no será verdad pero lo cierto es que con los crecimientos negativos que tenemos las políticas que se puedan llevar a cabo tendrán algún resultado darán oportunidades a alguna gente pero no resolverán en bruto eso es verdad

sin embargo no quiere decir que aunque su impacto se limitado no haya que hacer estas cosas además

esas acciones se puede comprobar su eficacia se orillan aquellas que no dan resultados y se incide en aquellas que resultan más útiles y más eficaces

nuestra enmienda decía que el parlamento debiera monitorizar un poco la marcha de todas estas cosas y aunque nosotros hablábamos de dos veces por periodo de sesiones al final queda en una lo cual es irrelevante

el departamento y el consejero tendrían que comparecer tantas veces lo pidan los grupos o sea que por lo tanto tampoco es pero aunque estas cosas no tienen las pnl las mociones no tienen desarrollo reglamentario

realizar una interpretación de lo que pretendemos esas sesiones debieran de ser no una mera comparecencia de estas habituales sino algo mucho más exhaustivo con una documentación

sería conveniente también que sus señorías visitaran a veces esas experiencias que se llevan en algunos lugares en fin algo más denso algo con carácter monográfico y que permita evaluar los resultados de las acciones seguidas y

a futuro y por último también decir que

el gobierno se nos antoja que por otra parte también presenta síntomas de cierta claudicación lo he dicho alguna otra vez en esta tribuna a presiones de naturaleza sindical que plantean legítimamente estrategias de confrontación pero

las que tienen los desempleados la que tienen las empresas y en general nuestra economía

consensos la búsqueda no fácil desde luego eso es conocido pero aunque sea de forma

consensos universales para efectivamente ir

aunque sea pequeños acuerdos fórmulas de consenso que permitan recuperar alguna confianza en los ciudadanos sobre que la administración y los poderes públicos de verdad están en una batalla en una ofensiva compartida en la búsqueda de soluciones para todo esto y décimos que hay esa claudicación porque

yo le invito al gobierno le invito al señor consejero a que en esa entente permanente que hay con todos los grupos colectivos y las presiones que cada cual ejerza

que las que vienen de determinado mundo sindical no favorecen a la economía vasca a los desempleados vascos y tampoco al gobierno nada más y muchas gracias eskerrik asko

denok ondo dakizuenez ere el empleo no se crea por decreto ni tan siquiera mediante ley señora llanos como todos ustedes además bien saben nadie tiene la varita mágica para crear empleo porque si así fuera no existirían problemas de empleo

y todos los partidos con representación en este parlamento tenemos responsabilidades de gobierno

ámbito a excepción de upyd que me lo está señalando el señor maneiro fíjese señora llanos el empleo no se crea por decreto pero

es la reforma laboral aprobada en el congreso con los únicos votos del partido popular y le recuerdo que la reforma se nos vendió como necesaria

lo cual no ha ocurrido sino más bien todo lo contrario por eso venimos defendiendo que la labor del gobierno es la creación de las condiciones y los estímulos precisos para la generación de nuevos empleos y mantenimiento de los existentes para ello es necesario por un lado

y la política de estímulo que incentive la actividad económica y coadyuve en la generación de empleo y por otro lado es imprescindible la colaboración entre las diversas instituciones

como ya he dicho con anterioridad el gobierno vasco lleva desde el primer día trabajando para generar el estímulo y la confianza que la economía necesitan en permanente interlocución

los departamentos de empleo y desarrollo económico del gobierno vasco aprobaron el programa de reactivación de empleo dos mil trece dos mil dieciséis el citado programa se presentó

solo tres meses escasos después de la constitución del gobierno por lo tanto por mucho que se empeñen en decir que el gobierno vasco está parado

diru partida zehatzekin además este documento de trabajo de acción directa a favor del empleo se presentó

el desarrollo de las acciones y los acuerdos interinstitucionales y políticos alcanzados en esta materia durante el presente año así como la evaluación de las acciones del programa de reactivación del empleo serán las que marquen la línea de acción del gobierno en materia de empleo a futuro

por dos motivos especialmente porque ya existe una previsión el gobierno y porque la ley por sí misma

el calendario legislativo presentado por el gobierno plantea la presentación de la ley de empleo para el primer semestre de dos mil quince entendemos que la futura ley por sí misma no es generadora de empleo ni tiene capacidad de transformar la coyuntura actual

no parece oportuno o al menos prioritario la vocación de la ley no será coyuntural serán los planes de gobierno a través de la acción responsable a la compleja situación de la economía en general y su traslación al empleo siendo la ley de gran relevancia entendemos que es oportuno y necesario un desarrollo reflexivo y ampliamente consensuado si de la aprobación de una ley dependiera la solución a la falta de empleo

que dicha ley ya se habría aprobado en este parlamento hace mucho tiempo y no me cabe la menor duda que en otros ámbitos institucionales también se habrían aprobado leyes de empleo

todos los grupos remando en la misma dirección para crear

para la regeneración de la actividad económica y creación de empleo azkenik eh bilduren botoa eskatzen dugu

gracias de nuevo señora presidenta bien yo creo que

los discursos de todos han sido muy parecidos

estoy bastante de acuerdo con el discurso que hoy ha hecho aquí y con algunas de las manifestaciones

no rehuimos en ningún caso ni debatir de la reforma laboral

en muchísimas ocasiones pero bueno yo creo que

de que no se trata de rehuir esos debates hoy el tema es otro el tema es decir

además nosotros lo dijimos desde un primer momento y al propio consejero yo se lo dije de forma privada creo que era bueno que el plan de empleo se hubiera traído

para que entre todos hubiéramos podido aportar lo que estimásemos conveniente para mejorar esos niveles de empleabilidad y para reducir el paro porque evidentemente al gobierno es al que le toca gestionar

pero creo que una aportación que todos los grupos aportemos

precisamente con ese objetivo común es bueno yo señor itxaso algunas de las cosas que ha dicho es que no se las he entendido ya me puede perdonar yo los datos no me los invento no es que sean ciertos o no es que son datos están ahí quiero decir a usted igual le gustaría coger otros pero los que yo di eran ciertos

aquí se ha comentado ya paso a lo que ha comentado el partido nacionalista vasco claro que el empleo no se crea por decreto si nosotros

absolutamente cierto pero también es cierto que tampoco se crea simplemente con planes

un plan curativo sino paliativo pues precisamente creemos que a lo mejor lo que hay que hacer

es que igual lo que hay que hacer es emprender una serie de reformas estructurales y de cambios estructurales para que eso se cambie

cambios que ha hecho el gobierno de españa van dirigidos precisamente a eso van dirigidos a que con una tasa de crecimiento menor

o en crecimiento negativo como decía usted

y lo que también hay que hacer es evidente que el empleo no lo crea el gobierno

fuera de esta sala y fuera de los despachos del gobierno pero para eso hay que crear las condiciones y entre otras cosas también hay que fomentar

que siempre ha tenido euskadi lo que no se puede hacer es culpabilizar a los empresarios como se hahecho por parte

porque el empleo es verdad que lo crea la sociedad y no se crea por decreto pero a nosotros nos corresponde poner las condiciones necesarias o aportar lo que estimemos conveniente precisamente para que ese empleo se cree

aquí se hablaba de la ley de empleo la ley de empleo no es una medida que hemos propuestos nosotros estaba como bien ha dicho en el calendario legislativo y

de la calidad y la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de las personas

precisamente porque nos parece un objetivo importante y nos parece una ley que puede servir para eso es por lo que nosotros solicitábamos

que se llevase a cabo cuanto antes creo que dentro de la agenda legislativa del gobierno debería de ser de las primeras precisamente

de crear empleo en esta comunidad y en el resto porque sí nos podemos comparar con otros pero también ya sabe que hay un refrán que dice señor itxaso de mal de muchos consuelo de tontos

yo represento a los vascos y yo quiero que en euskadi se cree empleo

pues sí pero es que yo estoy aquí para aportar ideas para aportar

y para controlar que el gobierno haga los deberes

y lleve bien esa política de empleo yo

usted ha dicho que no se trata de dar al gobierno qué más quisiéramos desde el grupo popular que ese plan hubiera tenido el éxito y los objetivos que se planteaban y lo veremos al final

para euskadi como usted dijo aquí se podrá analizar porque tiene elementos suficientes para poder analizar dicho plan

podremos aportar entre todos y es lo que solicitamos en esta enmienda de transacción

las medidas que como usted dijo sean necesarias para readecuar ese plan para llevar a cabo la readecuación de ese plan con esto quiero finalizar creo y se lo dije a usted

creo que no se trata de echar culpas creo que se trata de responsabilidades y

que para todos los grupos y para este gobierno el empleo debe ser la prioridad

gracias presidenta nos insiste el gobierno nos insiste el lehendakari nos insisten los distintos

en decirnos que la creación de empleo la salida de la crisis está en la agenda del partido nacionalista vasco y está en la agenda del gobierno vasco

este asunto que es el principal en la agenda del gobierno nos parece correcto que así sea pero queremos ver los resultados esto es lo que pedimos nosotros al gobierno

si estos resultados no son positivos sino que son incluso negativos la obligación nuestra es denunciarlo en fin como ustedes por ejemplo o nosotros mismos

del gobierno de españa u otro tipo de medidas que en los últimos tiempos ha venido tomando el último gobierno de españa o los anteriores efectivamente medidas equivocadas o que no han dado los resultados que en su momento cuando se presentaron en las correspondientes ruedas de prensa

lo que tienen que hacer los distintos grupos de la oposición o incluso lo que debería hacer el propio partido que sustenta al gobierno es analizar esos resultados y criticarlos

que el gobierno no está parado que está en marcha sí nosotros reconocemos que se han presentado cosas han presentado programas han presentado planes hay incluso acuerdos interinstitucionales

entre diferentes partidos políticos siempre se nos recuerda que el objetivo de esos planes de esos programas de esos decretos de esos acuerdos es la creación de empleo

lo lógico es que pidamos las explicaciones al máximo responsable que en este caso es el gobierno vasco y por lo tanto se trata de ser críticos y analizar

que escuche nuestras críticas que asuma nuestras críticas con deportividad que tome en cuenta nuestras aportaciones y que asuma su responsabilidad efectivamente se ha hablado de la ley vasca de empleo que ahora se nos dice que es una ley que no va a crear empleo por sí misma o que evidentemente

ni va a conseguir sacarnos de la crisis económica en la que nos encontramos pero yo iba a hacer lo mismo que ha hecho la señora llanos recordar qué es o cuál es el objeto principal

de euskadi cuya finalidad última es el incremento de los niveles de empleo de su estabilidad y calidad y la mejora de la empleabilidad y de la inserción laboral de las personas así como la regulación de las estructuras e instrumentos para planificar y desarrollar las políticas activas de empleo si ese es el objetivo primordial de la ley que el gobierno vasco ha incluido en su calendario legislativo lo lógico es pedirle al gobierno que traiga esta ley cuanto antes evidentemente que esta ley sea la mejor posible ni los planes ni los programas ni los decretos ni las leyes crean por sí mismos empleos pero sin embargo se nos venden así se nos presentan así

consejeros durante estos meses al gobierno sobre la cuestión del empleo siempre nos responden con la exposición de todos estos planes y programas y actuaciones

queremos ver los resultados y nosotros sí pensamos que la acción de cualquier gobierno y la acción también de este gobierno en la medida de sus posibilidades teniendo en cuenta cuáles

evidentemente puede ayudar a salir de la crisis económica y puede ayudar a crear empleo sin ningún tipo de dudas no hay varitas mágicas pero

pueden hacer muchísimas cosas para sacarnos de esta situación

y la responsabilidad principal es del gobierno vasco y tienen ustedes que asumir esa responsabilidad en todo caso si el gobierno vasco se ve impotente

de sacarnos de la crisis y crear empleo yo creo que sería interesante que lo reconozca y lo diga cuanto antes y si no lo hace y los resultados siguen siendo los que están siendo pues
la obligación de la oposición es recordárselo y nosotros lo haremos gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak

aclarar algún malentendido con la señora llanos proponente de este asunto mire yo creo que

se acredita de forma continuada y en el tiempo la coherencia y la consistencias de las ideas y yo le he planteado esa cuestión porque en un debate reciente ya utilizaba la misma técnica de aportar datos y usted me acusaba de demagogia

y lo hago saber precisamente para que en el futuro en cualquier otro debate ulterior no hagamos este tipo

de descalificaciones solo porque una técnica de argumentación tan elemental como aportar datos se trae aquí

que ya ha terminado la crisis que ya estamos

y sí en este momento están creciendo los enanos en la economía vasca porque las noticias de fagor la destrucción del

estado en fin la marcha de tubacex hay datos que desde luego no son ni mucho menos para muy optimistas y de todas maneras lo que aquí se ponía de relieve era

iniciativa de las políticas de empleo no era cuestión de hacer aquí fuegos de distracción porque podría haber acudido al tema de la reforma laboral que da bastante juego pero he querido centrar en el tema de las políticas de empleo que era la cuestión nuclear ley de empleo

nosotros a la hora de plantear enmiendas a su iniciativa

conturbar el calendario legislativo del gobierno porque entendemos que efectivamente lo que tiene que hacer es trabajar y en el debate que usted sostuvo con el consejero justamente le recordaba que el debates que han debido de tener en otro ámbito institucional el señor consejero utilizaba también la técnica de traer

las cuestiones dialécticas de control al gobierno o lo que fuera

poner las datas y las fechas de calendario que ya se han presentado cuando crea oportuno pero y aquí ya se ha dicho también por el señor maneiro

al gobierno y de impulso es decir control para ver qué es lo que haces si funciona bien si hace mal si lo que hace es simplemente colgarse medallas o realmente hace cosas eficaces y

ideas y sugerir acciones que puedan contribuir a mejorar esas políticas en concreto luego me ha sorprendido que en un tema de este calado

tiene muchas cosas que decir y de hecho las dice pero me ha sorprendido que ustedes hayan venido a este debate un debate

siquiera sin una enmienda eso puede obedecer a muchas razones yo no prejuzgo eso pero me parece que en sí mismo muestra como un

enmienda siquiera para entrar luego en el juego de las conversaciones posibles acuerdos que pueden ser o no o para mantener las disidencias eso

que suelen emplear mucho brío a la hora de plantear legítimamente denuncias al estado de cosas

no han hecho siquiera tampoco una enmienda en fin yo no pretendo afear ni mucho menos ese planteamiento porque aquí es cada uno muy dueño y señor pero creo que desde la legítima crítica política

y yo creo que no se corresponde con la importancia del tema

a la señora llanos agradecerle mucho más el tono de la segunda intervención que el de la primera y también al señor

el partido socialista como upyd incluso estamos de acuerdo en que lo que tenemos que hacer es debatir en la comisión intentar proponer ideas

que ha quedado claro que todos juntos podríamos aportar esas ideas e intentar remando en la misma dirección

y crear las condiciones para que se genere el empleo nos parece bien y estamos de acuerdo

plan de reactivación del empleo en la comisión como ha quedado claro con la enmienda transaccional que hemos firmado y con la enmienda

la menor duda ni el menor inconveniente en debatirlo y en que las ideas que pueda tener cualquiera de los grupos sean y siempre que sean positivas y en aras a conseguir el empleo aunque puedan ser

para entre todos generar las condiciones que nos lleven a la reactivación económica y a la creación de empleo que es el objetivo último de todos creo que también de eh bildu

respecto a en esto sí que nos estamos de acuerdo con usted señora llanos

la tasa de paro sigue siendo diez puntos superior en españa que en euskadi y algo también tendrá que ver

el partido nacionalista vasco ha tenido muchas y durante mucho tiempo responsabilidades de gobierno en este país por lo tanto no creo que pueda echar por la borda todos esos años de buena gestión del partido nacionalista vasco en aquellas instituciones en la que hemos gobernado respecto al tema de los datos que también evidentemente no son buenos y los datos datos son las cifras ahí están

pero omite otros que también se le recordaron aquí el día de la interpelación que a nuestro juicio también son importantes

permiten pensar que estamos empezando a remontar

de octubre no hubo decrecimiento económico se incrementó la afiliación a la seguridad social en cuanto a la construcción el sector de la construcción sector que ha sufrido la crisis muy especialmente y como muchas veces lo hemos recordado en esta tribuna

positivos creemos que en esto ha podido también tener que ver el plan renove

de analizar esos resultados cuando sean presentados en la comisión respecto al tema

le contestó el señor consejero que había descendido

el paro en el estado un dos coma ocho por ciento y en euskadi un once coma cuatro por ciento por lo tanto aunque sea poco pero parece que algo algo sí que empieza a mejorar

del gobierno es que en octubre también ha incrementado el número de empresas inscritas en la seguridad social por segundo mes consecutivo son pequeños datos que vienen

estamos en la senda o empezando a ir en la senda respecto al señor maneiro

para eso estamos hoy aquí para eso hemos firmado la enmienda transaccional para que esos resultados se nos presenten en la comisión de empleo y podamos

los resultados podernos pronunciar pero no hablar un poco de que si no han hecho que si entonces que igual si no tienen ideas etcétera yo creo que

debatir y hablar pero ya con los datos sobre la mesa al partido socialista le agradezco también creo que

del intentar el positivo ir aportando ideas

eskerrik asko berriro mahaiburu andrea yo voy a ser muy breve

en la primera intervención lo primero sí que

hacerle dos preguntas simplemente si el fijar esas condiciones que dice usted que es necesario fijar unas condiciones para

anunció ayer el señor de guindos en cuanto a las nuevas modificaciones en la reforma laboral o si vendrán dadas por el recorte presupuestario en inversión innovación y competitividad de la diputación de álava o si vendrán dadas por el recorte

la respuesta y es que no eso no fija esas condiciones

una de las prioridades es el empleo y como he dicho sobre todo el empleo de calidad no nos sirve el que se cree empleo en otros sitios o en otros estados sino que

que solamente el cinco por ciento de los nuevos contratos son contratos fijos y que las condiciones laborales cada vez son peores por lo tanto no le quepa duda de que para nosotros es una prioridad la creación de empleo

como digo todas las semanas estamos debatiendo iniciativas relacionadas con el empleo no le quepa duda tampoco de que seguiremos trayendo a esta cámara nuevas iniciativas nuevas propuestas concretas

simplemente no veíamos

se han definido programas concretos algunos muy concretos como decía antes la señora

con medidas propuestas objetivos fijados y números pero no entendemos que pueda ser la base para definir las nuevas estrategias de cara a crear

seguiremos debatiendo pero no este plan de reactivación no puede ser la base y respecto

una ley de empleo pero creemos que hay otras prioridades

las políticas pasivas de empleo que como hemos dicho aquí en numerosas ocasiones

no es imprescindible pero sí fundamental para hacer un marco propio de relaciones laborales

pedir la votación por puntos y en ese caso en el primero y en el tercero nos abstendríamos y en el segundo votaríamos a favor

anunció que así lo iban a hacer y también haremos todas nuestras aportaciones para mejorar ese plan de reactivación y empleo que creo que es importante y como digo aquí
todos tenemos que aportar eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea

es la propuesta que ha realizado el gobierno en lanbide que entre otras cosas supone el despido de más de doscientos trabajadores y trabajadoras ayer mismo movilizaciones en la calle de los colectivos afectados venían a decir lo que hoy estamos diciendo en esta cámara

entre plazas y puestos de trabajo y personas no ha habido relación de puestos de trabajo en lanbide

no lo hay todavía a día de hoy consolidar por medio de esta rpt un número insuficiente de puestos de trabajo para ofrecer

en muchos de los casos de la plantilla tampoco lo es y tampoco consolidar puestos que se han dado arbitrariamente

aurrekoan esan nuena errepikatuko dut estos doscientos trabajadores y trabajadoras son necesarias

de la renta de garantía de ingresos y para lanbide berrehun pertsona hauek dira diru sarrerak bermatzeko errenta kudeatzeko

hemen behar dut denuncia que lanbide le ha hecho perder un trabajo incluso de inclusión activa akatsen bidez

han sido suspendidas durante este año incumplimiento de obligaciones superar ingresos

pero no se dice que se han tenido que restituir que se han restituido

las agencias privadas cobrarán hasta hiru mila euros por recolocar a un desempleado horrelako gauzak gure herrian

hablábamos en el punto anterior de políticas activas de empleo

realmente eficaces útiles y que gestionen estas tareas con rendimientos importantes

que se plantea y que viene en la iniciativa es su grado

las necesidades que tenemos ahora mismo los servicios de empleo en general se caracterizan por hacer pues en fin toda una panoplia de programas

a eso se añaden programas locales de ayuntamientos y al final los usuarios perciben todo esto como una amalgama muy grande muy genérica que no tiene digamos

digamos para la necesidad puntual de la persona que tiene una necesidad entonces euskal herria bildu plantea una cuestión interesante

sobre lanbide del que también hemos hablado antes sobre el

y que realmente fue difícil y costoso poner en marcha que

un órgano de esta potencia tiene sus dificultades pero lo que plantea la iniciativa es si este servicio público realmente

a la medida de nuestras necesidades pues bien según el consejo económico y social

sobre qué efectivos tienen los diferentes servicios públicos de empleo por cada mil habitantes

nos encontramos con que en dinamarca tienen una media de cincuenta y seis coma dos efectivos por cada mil habitantes

no tiene tampoco mucho desempleo suecia tiene cuarenta y dos coma nueve reino unido treinta y tres coma tres

españa cuatro coma cuatro pero hablamos de lanbide entonces para dimensionar si los efectivos de lanbide son suficientes pues

desempleados que tenemos en este momento por ejemplo por una plantilla de novecientos nos darían unos efectivos de cinco por cada mil habitantes

si ese coeficiente si esa ratio es

entonces yo creo que estas comparaciones nos permiten situar realmente el servicio público de empleo lanbide en relación a países de referencia como los que he citado

claro evidentemente la comparación no se resiste estamos muy abajo muy abajo claro esto nos lleva también de nuevo un poco a lo que hablábamos antes en materia de políticas activas de empleo el programa de gobierno el programa de gobierno que nos planteaba

hablaba de mil días para gobernar tenía en materia de políticas activas de empleo cuatro objetivos el cuarto objetivo era el del diálogo social ya hemos visto que eso de momento tiene pocas posibilidades de cumplirse lanbide el nuevo lanbide que era el objetivo dos pues en fin empleando unas palabras que empleaba el propio consejero recientemente en la prensa escrita pues es un torpedo en la línea de flotación ponía el titular pues vaya sí que estamos bien con el nuevo lanbide

hay una nota que circula por ahí sobre el malestar que hay entre los empleados no sé si todos o parte

una vez que llega a conocimiento de uno pues en fin plantea el cuestionamiento yo no sé si es verdad o no es verdad que hay un importe de cincuenta y tres millónes

indebidamente entregadas y que por lo tanto están pendientes de reclamación y en esa nota que anda por ahí yo no soy muy partidario de dar crédito a las cosas pero

político al menos en esta cámara yo creo que tendría que aclararse realmente si estamos en esa situación porque si hay cincuenta y tres millónes en lanbide pendientes de cobro sería bueno que se supiera si es así o no y si es así qué medidas se van a adoptar recuperarlos por lo tanto lanbide efectivamente vemos que comparativamente tiene unos efectivos que están en el rango más bajo comparado con otros países europeos que por cierto tienen

mejores indicadores en materia de empleo y por lo tanto yo creo que esto siempre va a tener posibilidades de ser mejorado es verdad que siempre está

el dique presupuestario y los límites presupuestarios qué duda cabe pero respecto de la cuestión que plantea bildu sobre si estamos o no estamos yo creo que la comparación permite extraer conclusiones

en la enmienda que hacíamos a la moción de la que debo decirle señora arrondo que sí que tiene dos partes una la que tiene que ver con la mediación nosotros no podemos suscribirle eso por una razón muy simple

yo podría explicarle por qué pero si me permite voy a emplear el tiempo en otros menesteres y luego en cualquier momento en un aparte yo le explico por qué nuestro gobierno socialista hacía estas cosas la segunda parte tiene que ver con la rpt como decía en una enmienda

este tema se ha tratado anteriormente bueno se ha tratado anteriormente de tal suerte que hace cosa de más de un año en esta cámara salvo el que aquí les habla

ya sé que de nuevo vuelvo a sacar temas del pasado pero si entonces se podía hacer por qué ahora no se puede hacer porque entonces estaba todo el mundo de acuerdo bueno no nos hemos querido centrar en la cuestión de exigir plazos y tal porque como decía en el punto anterior aquí no venimos

pero lo que sí sabemos es que parte de las dificultades que tiene para llevar a cabo esa relación de puestos de trabajo y la valoración de dichos puestos pues es efectivamente ese conglomerado de diferentes procedencias que seguramente hace difícil articular esa relación

nos congratulamos de que haya sido recogido en la enmienda de transacción de que en todo caso esa relación de puestos de trabajo tenga en cuenta las condiciones laborales alcanzadas por los

de manera que si esto es así entendemos que bueno antes o después se formalizará dicha relación de puestos de trabajo

pero entendiendo que en esta transacción se logra al menos el propósito de nuestro grupo y es

las condiciones laborales que puedan tener los trabajadores que prestan su servicio en lanbide que como consecuencia de esos reajustes puedan suponer empeoramiento de sus condiciones laborales la enmienda de transacción así lo recoge y por eso nosotros nos congratulamos expresamos nuestra satisfacción por el acuerdo alcanzado

eta krisi ekonomiko honetatik ateratzea como decía hemos llegado a un acuerdo por lo menos cuatro grupos con representación en esta cámara en relación a esta iniciativa y a mí

importante nos parece que hoy después del debate de la propuesta en relación al empleo

acuerdo en relación al funcionamiento de lanbide pues tratamos un asunto de enorme trascendencia y un asunto que está

entre las prioridades más importantes de la ciudadanía vasca el gobierno vasco con la modificación aprobada en este parlamento de la ley

como todas sabemos asume asumió la gestión y tramitación de las prestaciones económicas previstas en la ley así como todo lo relativo a los convenios

uno de los principales objetivos de los poderes públicos y más en estos momentos de crisis económica es la creación o emprender todas aquellas acciones necesarias para la creación de empleo

el gobierno vasco como administración competente deben de ir orientados a la creación de empleo y a disminuir las tasas de desempleo existentes

en el país vasco no invitan para nada al optimismo el país vasco solo ha sido superado por asturias en cuanto al crecimiento anual del paro el aumento del paro en euskadi en porcentajes elevados más elevados que en otras comunidades autónomas y tenemos una tasa de actividad siete puntos por debajo de comunidades autónomas como madrid o doce puntos

yo le quiero hacer una matización al señor maneiro en relación a una referencia que ha hecho a propósito del debate anterior cuando decía que el gobierno vasco manifiesta en reiteradas ocasiones que cuando

van bien es por los méritos propios de ellos y especialmente lo dice el partido nacionalista vasco pero que cuando las cosas

por el lastre de la marca españa como también aquí nos ha dicho en esta tribuna en la mañana

yo no sé ahora qué va a decir o qué puede estar diciendo el gobierno vasco cuando vemos gracias a esa denostada reforma laboral y a otras tantas reformas

de lo que han hecho otros países cercanos y de la unión europea decía que no sé que puede decir este gobierno cuando vemos que el ritmo de destrucción de desempleo está siendo mayor que en otras comunidades autónomas cuando en otras comunidades autónomas vemos datos más optimistas

del gobierno vasco viendo esta realidad en cualquier caso está claro que el gobierno vasco se tiene que poner las pilas en esta cuestión y desde luego que

yo espero que no tenga esos discursos autocomplacientes que siempre ha tenido y sobre todo cuando ha apelado a que con un gobierno del partido nacionalista y con los nacionalistas siempre

por eso especialmente se pongan las pilas en esta cuestión y se pongan a trabajar y hacer los esfuerzos necesarios y que realmente sea la prioridad de este gobierno que no se enreden en otras cuestiones porque las

por lo tanto que no se enreden en otras cuestiones que tanto les gustan y sobre todo que no miren tan de cerca otras comunidades autónomas como parece que están mirando

de cataluña para ir en algunas cuestiones en la línea que se está planteando de desafíos

de lanbide servicio vasco de empleo van en el sentido de

a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras y a cubrir las necesidades de personal adaptada a los requerimientos de las empresas por ello el gobierno vasco es el que tiene la competencia de desarrollar planes programas y medidas y después de haberse materializado la transferencia de las políticas activas de empleo y su asunción por lanbide que a nuestro

ofrece una gran oportunidad ofrece la oportunidad de conectar de una vez por todas la percepción de las prestaciones económicas previstas en la ley con la empleabilidad porque a nuestro juicio toda política de inserción debe de ir orientada a la integración en el mercado de trabajo y por ello es necesario articular planes personales de búsqueda de empleo con el objetivo de asegurar la orientación profesional

un itinerario hacía el empleo decía el señor consejero en respuesta a esta interpelación

un modelo de seguimiento de la participación de beneficiarios de la rgi en las políticas activas y esto creo que es una cuestión muy importante y desde luego

a estar vigilantes a cómo es este modelo y a cuáles son los resultados hablando de resultados nosotros sí consideramos también que

hay que mejorar el funcionamiento de lanbide no lo dice solo el partido

de esta cámara en el propio informe del ararteko del año dos mil doce se hace referencia a esta cuestión y se habla del crecimiento de las quejas relacionadas con la gestión de las ayudas sociales y la lucha contra la exclusión

con el mal funcionamiento de lanbide son datos que obviamente conoce este gobierno el propio consejero era un informe con cuestiones muy concretas en relación

que queda de manifiesto como se dice que muchas de las quejas que han recibido han tenido que ver con el funcionamiento de los servicios en sus vertientes del sistema de gestión de demandas de empleo

y formación profesional me van a decir seguramente ustedes que cuando se realiza este informe ustedes no estaban en el gobierno pero claro

relativo del ararteko al dos mil trece no siga

pues ustedes desde luego tienen que hacer muchas cosas luego está la cuestión relativa a la rpt yo creo que esto es una asignatura pendiente aquí hay numerosos acuerdos en esta cámara que han instado tanto al ejecutivo anterior como a este ejecutivo es decir al ejecutivo del partido socialista como el ejecutivo del partido nacionalista vasco

la rpt de lanbide y no se ha realizado ha sido una tarea que no ha realizado el partido socialista que ya no está en el gobierno

que lleva gobernando por lo tanto creo que es una cuestión pendiente en esta nueva iniciativa a través del acuerdo alcanzado les instamos otra vez nuevamente

ya le hemos instando en alguna ocasión en esta legislatura que se elabore

dado que ustedes firman esta enmienda de transacción pues acuerden aprobar esa rpt de una vez por todas y lo hagan y desde luego esperemos que no tenga que pasar otro año llevan un año en el gobierno esperemos que no tenga que pasar otro año

ideas recogidas por el partido popular en su enmienda presentada en la iniciativa original están recogidas y en ese sentido bueno pues agradecer también la disposición
de los otros tres grupos que firmamos esta enmienda transaccionada muchas gracias eskerrik asko garrido andrea mistoa upyd taldearen

decir que votaremos a favor de la transaccional evidentemente la hemos firmado es un tema que se ha tratado en bastantes ocasiones en este parlamento y por lo tanto y
no tenemos nada más que decir salvo votar a favor de la transaccional eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aiartza jaunak dauka hitza

egokia bermatzeko pregunta que fue contundentemente contestada por el consejero diría más detalladamente desarrollada

desde la realidad y en aplicación de concretas soluciones pero antes de entrar en el análisis de las soluciones que en esta cámara fueron planteadas me gustaría volver atrás solo un momento y con la entrada que me ofrece la justificación que la señora arrondo utilizó en esta interpelación en concreto su referencia a la puesta en marcha de lanbide comentario que hoy ha vuelto a hacer la señora arrondo

recordar algunos detalles de ese proceso después de la negociación de transferencias políticas activas de empleo lanbide comienza su funcionamiento

lanbide es producto de tres herencias administrativas distintas tres culturas diferentes de concepción del servicio público de empleo

prácticas e incluso objetivos por un lado el antiguo inem servicio público de empleo estatal organismo autónomo de la

por otro la dirección de empleo del departamento de empleo y asuntos sociales del gobierno vasco y un tercer componente la sociedad pública egailan

pasa a ser organismo autónomo y acto seguido asume la competencia para la gestión de la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria de vivienda responsabilizándose de la competencia de tramitación resolución pago y control de las prestaciones de rgi

que estaban en manos de las diputaciones forales y los ayuntamientos después de este tortuoso proceso hoy lanbide precisa ser dotada de una estructura coherente

con efectividad a las demandas sociales de intermediación laboral así como de impulso de la cohesión social y la lucha contra

y la exclusión ese viernes el consejero aburto realizó un ejercicio de responsabilidad dejando al margen valoraciones y afinidades un ejercicio de responsabilidad con el planteamiento de soluciones para hacer de lanbide servicio vasco de empleo un organismo autónomo de nuestra administración pública pero un organismo que funcione la solución se materializaba referida fundamentalmente a dos actuaciones relevantes dos claves

con su compromiso de ser presentado en esta cámara en breve será momento de posterior debate como usted

en su intervención y la segunda la relación de puestos de trabajo prevista desde la propia constitución de lanbide

que posteriormente comentaré no ha restado nada a las actuaciones de mejora día a día a las actuaciones de mejora llevadas a cabo durante estos meses en lanbide el consejero las desarrollaba

y es a mí juicio interesante solamente recordarlas en el área de atención e información a los usuarios las acciones específicas para oficinas con mayor demora

el plan de colaboración con administraciones con otras administraciones y entidades el control de calidad en la atención en el área de tramitación y resolución la simplificación de la tramitación la reducción del número de documentos los procesos de intercambio electrónico de información entre administraciones

el plan de control de calidad de resoluciones la planificación de los procedimientos periódicos de revisión en el área de verificación y control

la implantación de medios informáticos de detección de regularidades el desarrollo de vías de colaboración institucional

en el área de notificaciones las acciones correctoras sobre procedimiento común de tratamiento de la información la habilitación del procedimiento de notificación en mano en el área de pago y gestión económica el procedimiento de pago por incidencias reparando errores sin esperar al cierre mensual en el área de la vinculación con la activación

los planes específicos de reinserción con personas en situación irregular el fomento de la participación para la reinserción laboral de personas en empleabilidad muy baja el modelo de seguimiento de beneficiarios

nos trasladaba también un dato a modo de ejemplo

tramitados en plazo que estaban por debajo del entorno del cincuenta por ciento en enero elevándose al entorno del ochenta por ciento actualmente reconociendo aún así que hay que seguir mejorando sin pausa que el objetivo

quiero dejar con esto constancia de la laboriosidad en el día a día de lanbide

y referido a la actividad sí quería hacer referencia

funciona en lanbide no podemos perder de vista como comentaba anteriormente

las dos relevantes actuaciones que determinarán a futuro la actuación del servicio por un lado el plan estratégico herramienta en la cual se ha podido participar a través de irekia y como ocurre con estas herramientas y partiendo del diagnóstico en la situación actual se convertirá en instrumento clave

así como impulso a la cohesión social y a la lucha contra la pobreza y la exclusión en esto

momento por otro la relación de puestos de trabajo elemento de elevada complejidad y haciendo referencia al comentario que se hacía sobre el tiempo

comentario que hacia el señor itxaso y la señora garrido también yo de temas de agricultura conozco la verdad que poco

pero sí que llego sí que llego a entender que un árbol de un año es fácil de corregir

si está torcido pero un árbol de cuatro años es un poco más difícil referido a los tiempos

es de quinientos setenta y cinco personas pero hay trabajando hasta novecientos en estos momentos

y otros con la categoría de interinos de programa por tanto sujetos a temporalidad y sin ocupar plaza presupuestaria trabajadores

realizaba en este sentido el consejero un ajustado análisis entendiendo que en cuanto la situación económica mejore la necesidad

al haber menos personas para atender evidentemente aplicando a esta reflexión un estricto principio de responsabilidad

no sería una medida acertada a futuro el resultado de esta reflexión

de ochocientos catorce puestos de trabajo se pasaría por tanto de quinientos setenta y cinco a ochocientos catorce

una evidente reducción de la temporalidad además se contaría con un programa de apoyo inicialmente de ochenta y seis personas que fluctuaría en función de dos variables el número de personas receptoras de rgi y la tasa de desempleo

habla usted de trampas señora arrondo aquí no hay trampas la cobertura de estos puestos se realizará ajustándose a la normativa vigente

contaríamos con novecientos personas dando servicio en lanbide no hay trampas señora arrondo lo que aquí hay en resumen es análisis y reflexión responsabilidad en la toma de decisiones y aplicación de soluciones concretas besterik ez eskerrik asko

luego habría una fluctuación según el número de perceptores hablaba de cada cinco mil nuevos perceptores de rgi se incorporarían y tal bueno este año ha habido más de cinco mil nuevos perceptores en la rgi

no se ha aumentado plantilla no puede ser un criterio único y exclusivo para fijar cuál es la plantilla por lo menos mínima que debe de tener lanbide y nosotros defendemos que la actual plantilla es por lo menos mínima

en estos momentos al señor itxaso jauna

en la situación que vive hoy lanbide y también en la situación de la no existencia de la relación de puestos de trabajo por lo tanto entiendo que de alguna manera se vaya en este debate un poco por la tangente intentando escurrir un poco también el bulto

en este caso por lo menos son compartidas eta bukatzeko aipatuko dut beste talde guztiak aurkeztutako erdibidekoaren kontra bozkatuko dugula

naturalmente que sí de todas todas pero lo que hemos puesto de manifiesto en la primera intervención es que hubo dificultades para poner en marcha lanbide yo no sé si a usted le ha quedado claro qué tipo de dificultades hubo y de qué naturaleza fueron por una parte

la tesis pero es que lo hubo y luego poner en marcha ex novo un órgano de esta naturaleza y de esta dimensión no es fácil no es fácil ni para este gobierno ni para el anterior lo que hemos puesto de manifiesto

y nosotros también queremos decir que de conformidad con lo dicho en el punto anterior en el que he intervenido que nosotros no venimos a dar cera al gobierno por darle

de emplazar a unos tiempos breves para obligar al gobierno no

hemos puesto el acento básicamente en hacer una comparación sobre dimensiones de los servicios públicos de empleo al punto de que hay incluso una coincidencia

porque ustedes demandan la insuficiencia de medios y nosotros en este estudio comparativo ponemos de relieve que efectivamente hay servicios públicos de empleo notablemente mejores

lo de los plazos y lo de los tiempos nosotros hemos hecho dejación de todo ello casi con toda seguridad usted antes

y estudiando este tema habrá visto los antecedentes y habrá visto que cosas se dijeron también por parte de su grupo y supongo que eso le habrá creado también algún problema a la hora de plantear cuál iba a ser su discurso porque efectivamente la contraparte en este caso yo

para soltarme la melena pero no nosotros estamos en actitud constructiva por supuesto lógicamente con la quirurgia fiscalizar que las cosas se hagan en los términos que aquí se mandatan los acuerdos que aquí salen que tengan el mejor rendimiento la mejor utilidad los mejores resultados y razonablemente ver aquellas fórmulas que son atinadas y aquellas que no pues censurarlas criticarlas y cuando hay también anomalías como a todo gobierno

yo estoy convencido de que lanbide antes o después será un buen servicio vasco de empleo con

pero lógicamente el camino no es fácil yo lo que le pido al gobierno igual que antes es que lleve a cabo con mesura esa relación de puestos de trabajo que

menoscabar derechos laborales de trabajadores o de algunos trabajadores y como el acuerdo que hemos alcanzado parece que

destierra esa posibilidad pues estamos tan contentos entonces nada más muchas gracias y agradecer a los grupos

aclarar que estas cuestiones que usted censura seguramente también con razón nosotros las entendemos desde el punto de vista lo digo así de forma

a toda la sociedad a todos los agentes a todos los operadores y a toda aquella entidad que trabaje en el ámbito del trabajo y del empleo

es verdad que nosotros compartimos la tesis de unos servicios públicos fuertes pero eso no destierra para nada la posibilidad de colaborar con otras entidades que permitan obtener resultados porque al final esto no es una cuestión teórica sobre si lo público o lo privado la cuestión es conseguir
que la gente tenga oportunidades para trabajar y para eso no hay que andar tampoco con paños calientes eskerrik asko itxaso jauna euskal talde popularraren

me alegro sinceramente de que reconozca mejoras realmente me alegro

sí quería comentar lo que representa la solución que se nos plantea es un planteamiento primordial de garantía del servicio

una garantía del servicio una plantilla estructural adecuada óptima

como ocurre en el momento actual un programa de apoyo y cumpliendo la ley realmente cuando todo esto está garantizado yo no veo el problema y cuando usted se refiere

lo demás es que no veo el problema respecto al señor itxaso

la actitud de positiva de colaboración del señor itxaso

y en cualquier caso hoy hemos dado un gran paso con la enmienda transaccional que hemos firmado acuerdo consenso

de soluciones y yo desde aquí a pesar de su anuncio le animaría a sumarse a este camino eskerrik asko